atalari ekingo diot aurrena besteak baino lehenago pues no es la primera vez que

para explicarles los contenidos del proyecto de ley municipal que este gobierno remitió a la cámara hace ya ocho meses lo hice

en una serie de contactos bilaterales que encabezando a un grupo del departamento que tengo el honor de dirigir

todos y cada uno de los grupos parlamentarios que integran la cámara y lo volvía a hacer más recientemente el diez de diciembre del año dos mil catorce con motivo de una comparecencia que llevé a cabo en la comisión de instituciones seguridad y justicia

prolija que duró aproximadamente tres horas y donde ya en torno no a un anteproyecto sino que era en torno a un texto que había sido formalmente aprobado por el ejecutivo y remitido a la cámara estaba ya registrado en la cámara tuve ocasión

aportaciones y reflexiones que tuvieron a bien hacer los grupos parlamentarios creo que estos antecedentes el hecho de haber

me exime de la necesidad de reproducir ahora aquí datos informaciones reflexiones y consideraciones

y compartidas con los grupos parlamentarios y creo francamente que no es necesario

me limitaré por tanto en este punto a hacer una consideración general y de la manera telegráfica en relación a lo que considero lo más destacable del proyecto de ley que está en la cámara el primer dato que me gustaría destacar es el hecho de que el texto que tienen ustedes en la cámara no es el texto original del gobierno el texto original del gobierno

el ejecutivo lo sometió a la consideración del consejo

y el consejo municipal de euskadi constituyó un grupo de trabajo para analizar el contenido del texto original remitido por el gobierno y

el mínimo disenso posible en relación con el

el grupo trabajó intensamente durante los meses de abril mayo

y aprobó finalmente un texto que es el que después de la fase de alegaciones y de informes ha sido

durante ese proceso experimentó numerosas modificaciones existe un control de cambios exhaustivo que pone de manifiesto todas las alegaciones que hicieron los representantes de los diferentes niveles institucionales en la comisión municipal de euskadi y

objetivo que se perseguía la búsqueda de puntos de encuentro o la minimización de discrepancias se puede asegurar que se consiguió en buena medida

de que efectivamente se logró resultados efectivos en la maximización de consensos y en la minimización de disensos está en el hecho de que transcurrido el plazo legalmente establecido para ello

de los órganos forales legitimados para interponer cuestiones de competencia ante la comisión arbitral

por tanto podemos decir que este no es el primer proyecto ley que el gobierno remite a la cámara en materia de regulación del ámbito municipal de euskadi pero sí es el primero y el único que habiendo sido remitido por el gobierno a la cámara no ha sido objeto de ninguna cuestión competencial ante la comisión

el objetivo fundamental del proyecto ley es el de dotar al municipio vasco de un nivel de autonomía local

de las comunidades autónomas del estado español es decir que la autonomía local de los municipios vascos sea mayor que la de los municipios de cualquier otra comunidad autónoma del estado y esto se logra efectivamente a través de dos procedimientos por un parte a través de la determinación de un

si ustedes comparan el listado de ámbitos materiales que aparece recogido en el artículo diecisiete del proyecto que relaciona

y lo comparan con el listado recogido en el artículo veinticinco apartado primero de la ley de bases de régimen local que recoge la misma cuestión las competencias las materias en las que los municipios del estado podrán tener competencias

del proyecto que tienen a su disposición que la cámara va a analizar a partir de hoy es mucho mayor es notablemente más amplio que el de las competencias propias

de la ley de bases de régimen local lo cual significa de entrada que el ámbito material sobre el que los municipios vascos podrán ejercer competencias propias es mayor

de un mayor nivel de autonomía local para los municipios vascos pero es que además el proyecto de ley reconoce a los municipios vascos el derecho a participar activamente

los procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general que afecten

competencias propias sea los que se tramiten a nivel autonómico o las que se tramiten a nivel foral algo que es inédito en el panorama comparado autonómico del estado español y reconoce también a los municipios vascos la capacidad de estar presentes en los foros interinstitucionales en los que se adoptan decisiones sobre su financiación

por todo esto creemos claramente que el proyecto de ley que el gobierno ha remitido a la cámara es un proyecto de ley que garantiza que permite si finalmente entrara en vigor permite al municipio vasco gozar

local superior al reconocido por las normas básicas del estado para los municipios del conjunto de las comunidades autónomas no es que lo diga el gobierno solamente recientemente en

un foro académico constituido en bilbao en torno a este y otros aspectos de la cuestión municipal una persona de referencia en el ámbito académico

reconocido en el ámbito del régimen municipal decía

en referencia al proyecto de ley municipal que el gobierno ha remitido a la cámara que constituirá sin duda

la referencia máxima de reconocimiento de autonomía local entre el panorama legislativo comparado autonómico hasta ahora

privilegio a partir de ahora dirá si esta ley finalmente se aprueba será la ley vasca sin ningún tipo de dudas por el ámbito competencial que reconoce al municipio

participar directa y activamente en los procedimientos de elaboración de disposiciones generales que les afectan que afectan a sus competencia propias y por la capacidad sobre todo de manera especial esta sí

en los que se adoptan las decisiones que afectan a su financiación por lo que se refiere ya en la segunda parte de mi intervención a la enmienda a la totalidad que hoy va a ser objeto de debate y votación

la formación política que encarna en la cámara y el planteamiento que hace la enmienda bueno la persona que presenta la enmienda a la totalidad

que como todos los que integran la cámara merece el máximo de los respetos y la máxima consideración por supuesto en el ejercicio legítimo que hace de su

pero es también hay que dejar constancia de ello un parlamentario de una formación política cuya impronta en el ámbito municipal vasco queda claramente reflejada en el hecho de que

entre los dos mil seiscientos treinta y tres concejales que fueron elegidos el veinticuatro de mayo entre los doscientos cincuenta y uno municipios vascos

su impronta su peso su ascendiente en el entorno al municipio vasco y en el municipio vasco aparece claramente reflejado ese dato el veinticuatro de mayo se eligieron dos mil seiscientos treinta y tres concejales en doscientos cincuenta y uno municipios y la formación política a la que pertenece

no obtuvo ni un solo concejal de todos los que eran objeto de representación

después qué es lo que exactamente impugna pues basta una

que ha registrado en la cámara para articular a través de el la enmienda a la totalidad para poner de manifiesto que sin perjuicio de algunas discrepancias que mantiene y expresa en relación con el contenido

en el conjunto del sistema institucional vasco un conjunto un sistema institucional vasco que no depende ni fundamental ni exclusivamente por supuesto de la regulación que se establezca en la ley municipal sino que depende básicamente de lo que al respecto disponen básicamente la constitución la propia constitución

si el objetivo es cambiar alterar el sistema institucional vasco en su conjunto el instrumento idóneo para esto

ley municipal que no necesariamente inevitablemente tiene que operar en el marco institucional que está definido ya por las normas superiores por la constitución y el estatuto

concluir mi intervención con una reflexión sobre la expectativa que le resta al proyecto de ley a lo largo de su tramitación durante las próximas semanas o meses en la cámara ya he dicho antes que el proyecto de ley municipal que el gobierno ha remitido a la cámara es fruto del esfuerzo de minimización de disensos

pese a ello los grupos parlamentarios han registrado cuatrocientos cincuenta y uno enmiendas parciales que reflejan esto es evidente basta con una superficial lectura de las mismas reflejan puntos de vista no ya distintos sino antagónicos absolutamente irreconciliables

en un solo texto consensuado resulta poco menos que imposible dada la distancia sideral que existe entre los planteamientos que

formuladas y registradas por los otros va hacer falta por tanto un esfuerzo inmenso

de aproximación por parte de todos el gobierno está por la labor de procurar ayuda esforzarse en la búsqueda de estos puntos de encuentro pero creo que inevitablemente dada la distancia enorme existente entre las posiciones defendidas por unos y otros grupos parlamentarios entorno al proyecto de ley

de flexibilidad y de aproximación por parte de todos en el debate sobre el régimen municipal en euskadi suele ser habitual que confluyan dos perspectivas distintas la foralista y la municipalista

abiertamente enfrentados es decir quien defiende posiciones municipalistas lo hace desde el antiforalismo y quienes defienden posiciones foralistas lo suelen hacer desde el antimunicipalismo

es ambas cosas es municipalista y es foralista y no puede ser de otra manera mientras la constitución sea la que es y mientras el estatuto de gernika es el que es

de autonomía local superior al de los municipios de cualquier otra comunidad autónoma y es foralista como no puede ser de otra manera y así lo refleja además el hecho de que

de competencia por ninguna diputación foral ante la comisión arbitral

y el estatuto de gernika siga siendo el que es se puede modificar pero

a analizar si la ley vulnera la autonomía local cosa que no creo que haga o vulnera la autonomía foral que está garantizada constitucionalmente el gobierno insisto

entre los diferentes bienes jurídicos que entran en juego a la hora de aprobar la ley el municipalismo el foralismo y el autonomismo también y lo hará con responsabilidad con sentido común

agradecerán a la cámara la pronta aprobación de una ley que definirá definitivamente su ámbito competencial de actuación

situará al municipio vasco en el contexto institucional vasco eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna mistoa upyd taldearen

presidenta buenos días a todas y a todos buenos días señor lehendakari señor

consejera expresaré en mi primera frase

fundamental por la que presentamos en su momento y defiendo hoy esta enmienda de totalidad al proyecto de ley municipal porque esta ley no aporta nada relevante y las leyes en nuestra opinión deben ser y servir para transformar la realidad y para mejorar la vida de la gente no para dejar todo básicamente como está

no aporta nada relevante y además consolidad el entramado institucional vasco que nosotros queremos

esta es básicamente la razón fundamental por la que nosotros presentamos esta enmienda de totalidad porque lo que se pretende es consolidar el entramado institucional vasco en lugar de impulsar efectivamente todas las reformas legales que sean necesarias para cambiar profundamente este

no pretendemos por lo tanto con la presentación de esta enmienda de totalidad poner ninguna traba al gobierno ni a la aprobación de una ley municipal no queremos retrasar los trabajos que deben llevarse a cabo

lo que evidentemente no queremos hacer es mirar para otro lado de ahí

esta enmienda de totalidad por lo tanto es una enmienda de totalidad que se presenta con ánimo constructivo para decir que en este parlamento al menos hay un grupo político que no comparte en absoluto el proyecto de ley municipal que se ha traído y lo que pretende decirle al gobierno es en fin

un proyecto mejor mucho más ambicioso y además mientras tanto defienda usted como gobierno todos los cambios legales que sean necesarios para cambiar entramado institucional que padecemos este es por lo tanto el objetivo de nuestras enmiendas parciales y de nuestra enmienda de totalidad por lo tanto analizado el contenido del proyecto de ley municipal de euskadi presentado por este gobierno presentamos esta enmienda de totalidad porque el gobierno vasco pretende con este proyecto de ley

se expresa literalmente en él culminar

y completar el edificio institucional vasco en lugar de pretender reformarlo profundamente

y leo literalmente la compleja arquitectura institucional vasca y el régimen económico financiero de la comunidad y de sus territorios históricos

de la constitución y la ley del concierto económico así como del resto de normativa que ha procedido a la actualización de los derechos históricos vascos

los intereses reales de los ciudadanos y en consecuencia defender e impulsar previamente su modernización y su reforma esto que se ha negado permanentemente a hacer

esto que todos los gobiernos en los últimos tiempos se han negado permanentemente a hacer a modernizar nuestra estructura empezando por la constitución española

la ley de territorios históricos la ley de concierto económico y todo lo demás todo eso es lo que profundamente nosotros queremos cambiar nosotros pensamos que hay que cambiar todo eso que el gobierno vasco reivindica y pretende consolidar presentamos enmienda de totalidad porque el gobierno pretende convertir la ley municipal tal como literalmente se señala en norma actualizadora de los derechos históricos en materia local derivados del régimen foral vasco en lugar de actualizar y modernizar

institucional vasco con todas las actuaciones políticas y reformas legales que sean necesarias presentamos enmienda de totalidad porque el gobierno subraya que el proyecto de ley respeta escrupulosamente la singular posición que asumen los territorios históricos en el entramado institucional vasco en lugar de subrayar la necesidad de avanzar en su modernización simplificación y reforma como forma de que los ciudadanos vascos podamos disponer

acorde a nuestras necesidades y presentamos enmienda de totalidad porque este proyecto de ley en definitiva pretende consolidar el disparatado ineficaz

mientras que upyd considera que su reforma y modernización es urgente e indispensable por cierto como decía al principio presentar una enmienda de totalidad a un proyecto de ley que no cambia ni mejora nada y que no supone ningún avance relevante no es boicotear

simplemente luchamos por llevar nuestras ideas al plano legislativo

son los que han sido incapaces de traer una ley municipal mínimamente decente al parlamento vasco en treinta y cinco años o los que simplemente entienden la política como

y reparto de cargos en lugar de entenderla como lo que realmente debería ser transformación cambio y renovación así entendemos nosotros la política

para mantener los privilegios de algunos para que nada cambie sino que lo que debe ser y debe servir es para transformar la realidad para modernizarnos también en este caso upyd por lo tanto cree en la política que transforma en la política que regenera en la política que lucha por cambiar las viejas estructuras

a las necesidades de los ciudadanos en fin si hemos esperado más de treinta años para tener una ley municipal podemos esperar

hoy al gobierno vasco queremos decirle que esta no es la ley que necesita la sociedad vasca efectivamente es importante que euskadi tenga una ley municipal

parlamento lo hemos apuntado en innumerables ocasiones pero una ley municipal que fije clara y definitivamente las competencias a asumir

una ley municipal para garantizar la autosuficiencia financiera de las entidades locales una ley municipal para reformar y modernizar la estructura de nuestra administración local

como institución más cercana a los ciudadanos que puede realizar un papel esencial en la satisfacción de las necesidades más sensibles y relevantes una ley municipal que impulse también la fusión de los municipios más reducidos tal como hemos venido reclamando en absoluta soledad durante todos estos años en este parlamento y también en el congreso de los diputados

la participación ciudadana y la máxima transparencia sin embargo este proyecto no supone ningún avance ni cambia nada relevante y además consolida el absurdo entramado institucional vasco porque

y lo reitero nuevamente que una comunidad autónoma como euskadi de apenas dos millónes de habitantes disponga de cuatro parlamentos de cuatro gobiernos de tres haciendas de tres políticas fiscales distintas o de doscientos cincuenta y uno municipios esto es algo

que antes o después deberá cambiar y nosotros queremos cambiarlo y evidentemente aprovechamos también esta oportunidad para poder reivindicarlo doscientos cincuenta y uno municipios

el noventa y cuatro por ciento de los municipios alaveses y las dos terceras partes de los vizcaínos y guipuzcoanos

dos municipios vascos tienen menos de cien habitantes veintiuno están entre los ciento uno y los doscientos cincuenta residentes setenta y ocho tienen entre doscientos cincuenta y uno

solo sesenta y siete ayuntamientos vascos sobrepasan

habitantes el número mínimo que el consejo de europa considera necesario para prestar servicios adecuados

habitantes la magnitud que diversos estudios establecen como umbral de eficacia para la prestación esto es también el mapa municipal vasco que nosotros queremos cambiar profundamente la organización municipal y provincial de españa tiene su origen en el primer tercio del siglo diecinueve han pasado dos siglos y algunas cosas siguen también esta mantenemos en lo local una estructura institucional prácticamente idéntica a la que teníamos hace doscientos años lo cuál en fin no parece que tenga sentido

en todos estos años ni siquiera la constitución de mil novecientos setenta y ocho introdujo cambios en la estructura local e incluso se ha retrocedido ya que se han producido

en euskadi y mientras esto está así los diferentes gobiernos parece que se mantienen de brazos cruzados no proponen ningún cambio relevante

y nosotros queremos cambiar esto profundamente el tamaño y la población de los municipios ha demostrado que es una fuente más de desigualdad para los ciudadanos que dependiendo de dónde residen disponen y disfrutan de mayores y mejores servicios públicos y este es un hecho comprobado

en función del municipio donde uno viva o donde

y en el desarrollo de otras prestaciones nuevas cada vez más necesarias en la sociedad actual para facilitar la convivencia y promover el desarrollo social

el elevado coste el incremento de unas exigencias mínimas de calidad o la escasa población vecinal en muchas zonas son algunas de las causas que ponen de manifiesto la necesidad de reconsiderar

un proceso de fusión de municipios que esta ley evidentemente no recoge muchísimos países europeos han avanzado ya en ese sentido ya lo han hecho en los últimos años se han producido en las últimas décadas fusiones municipales en alemania

en dinamarca que suprimió en un momento determinado el noventa por ciento de los municipios

holanda suecia prácticamente todos los países europeos

de unir de fusionar municipios con el objetivo de prestar mejores servicios públicos al conjunto de la ciudadanía en españa esto no se ha hecho no cambia se mantienen todas las estructuras igual que hace décadas y en euskadi también y nosotros

hay que cambiarlo y efectivamente upyd plantea una profunda reforma de este entramado además de proceder a un ambicioso proceso de fusión de municipios

abogamos por la supresión de las juntas generales de los territorios históricos y de las diputaciones forales estas medidas traerían enormes ventajas relacionadas con la igualdad la prestación de servicios o la transparencia en ese nuevo escenario habría que proceder a impulsar

constitucionales para alcanzar una nueva distribución de competencias entre europa gobierno de españa comunidades autónomas y municipios fusionados

habitantes pero este proyecto de ley municipal presentado por el gobierno descarta también la fusión de municipios y desaprovecha una oportunidad histórica para iniciar ese proceso además no se actualizan las singularidades históricas viejas reliquias del pasado que nos lastran

a varias entidades es decir lejos de ordenar el entramado institucional

y se ratifica su crecimiento desmesurado este proyecto

podríamos compartir pero que en absoluto cumple señala una serie de objetivos que pueden estar bien pero si se lee en profundidad la ley se llega rápidamente a la conclusión que ni uno solo de esos objetivos

pensamos que deben cumplirse así habla de clarificación competencial habla de reforzamiento del papel institucional del municipio habla de financiación adecuada habla de dotar al municipio vasco de un amplio abanico de poderes habla de fortalecer las instituciones locales y reconocer a los municipios vascos un nivel satisfactorio de autonomía local o habla de fortalecer los instrumentos de acceso a la información y la participación ciudadana en el diseño decisión e implantación

locales señala esos objetivos pero no hace prácticamente nada para poder alcanzarlos efectivamente parece que este proyecto lo que trata de hacer es contentar a unos y otros grupos de esta cámara y eso está bien que un gobierno pretenda hacer para que

lo que pasa que nosotros pensamos que no basta con que se aprueben leyes las leyes que se aprueben tienen que ser buenas y tienen que cambiar muchas cosas y tienen que modificar la realidad y en ese sentido este proyecto de ley es profundamente conservador se consolidan las todopoderosas diputaciones forales no se lleva a cabo una

municipales no se garantiza en nuestra opinión la autonomía municipal no se garantiza la igualdad de los ciudadanos vascos independientemente del municipio donde residan eso sí se crea o se pretende crear un nuevo escalón de amigos del partido

las jefaturas de área en los ayuntamientos en fin y muchas cosas más que nosotros evidentemente no compartimos nosotros seguiremos defendiendo una ley municipal que impulse la fusión de los municipios más reducidos del modo en que se ha hecho en la práctica totalidad de los países de nuestro entorno

con el objetivo de servir y atender mejor a los ciudadanos y ser más eficientes una ley municipal para reforzar

y asegurar una financiación adecuada y la autonomía municipal una ley municipal para fortalecer los instrumentos de acceso a la información y la participación ciudadana y una ley municipal que incorpore medidas avanzadas de transparencia en el ámbito sin embargo este proyecto de ley no cumple los principales objetivos señalados y es por ello que pedimos su devolución al gobierno vasco como digo

profundamente conservador en el sentido de que mantiene lo que ya tenemos y apuntala justifica legitima el disparatado entramado institucional vasco que nosotros queremos reformar y tal decisión es profundamente perjudicial para los intereses de los ciudadanos vascos que ven desperdiciada una nueva ocasión

sus instituciones y su compleja arquitectura institucional por todo esto nosotros pedimos la devolución de este proyecto de ley al gobierno para que mientras tanto defienda todos los cambios legales que sean necesarios para modernizarnos internamente y nos presente más adelante una verdadera ley municipal

para culminar el proceso de articulación entre los tres niveles institucionales del gobierno de euskadi y es urgente

y ello a pesar de que gracias a las negociaciones del partido nacionalista vasco

introducir diversas disposiciones adicionales para salvaguardar la singularidad de nuestro sistema institucional ese que a usted no le gusta señor maneiro lo que nos va a permitir configurar un régimen local propio que nada tiene que ver con los municipios del régimen común como decía el señor erkoreka en lo que se refiere a la competencial y al régimen económico financiero lo cual para nosotros sí que es relevante señor maneiro y creemos que mejora sustancialmente la situación de nuestros ayuntamientos a lo planteado por la legislación básica del estado por ello estamos ante

el proyecto de ley municipal vasca en consejo de gobierno e once de noviembre del dos mil catorce su inmediata remisión a esta cámara y su presentación

el diez de diciembre del pasado año este proyecto de ley es fruto de un importante proceso abierto y participativo a través del consejo municipal de euskadi

de las diversas instituciones afectadas que representaban importante esto representaban al mismo tiempo las principales sensibilidades políticas existentes

convendrá conmigo que el trabajo era complejo ya que es necesario buscar un equilibrio

puede tener pretensiones legítimas de tener las mayores competencias y los mayores poderes frente a los otros y

se ha conseguido un punto de equilibrio inicial que entre todos debemos conservar y así evitar posibles problemas que hagan poco eficaz la virtualidad de esa ley en el momento que se apruebe como decía el señor erkoreka y también como no podía ser de otra manera ha de respetar el marco jurídico constitucional actualmente vigente que a veces usted parece que desconoce es decir para

nos dice aquí pues es necesario hacer modificaciones que también ha hecho referencia a la reforma constitucional pero plantéense donde es su lugar adecuado para ello se trata por tanto de una ley integral porque regula dos aspectos básicos de la autonomía local de la autonomía municipal las competencias de los ayuntamientos y su financiación algo que nunca se ha hecho en otra comunidad autónoma del estado se pretende y creemos que se consigue

y no unos meros servidores o prestadores de servicios además de establecer novedosos sistemas de participación y colaboración interinstitucional que también

vamos a votar en contra de su enmienda a la totalidad porque precisamente las razones que usted esgrime en su justificación para presentar la enmienda de totalidad para nosotros constituyen gran parte de la virtualidad de este proyecto de ley dice por qué este proyecto de ley se pretende culminar con este proyecto de ley

y completar el edificio institucional vasco efectivamente señor maneiro es una ley necesaria para contribuir al cierre de la articulación del sistema institucional vasco tras el estatuto de gernika y la ley de territorios históricos cierra el círculo de institucionalización interna

dice también porque no tiene en cuenta perdón porque tiene en cuenta como no podía ser de otra manera la compleja arquitectura institucional vasca y el régimen económico financiero de la comunidad

económico es precisamente este sistema jurídico político pactado con el estado señor maneiro el que nos ha permitido

logradas en materia de autogobierno y de desarrollo de políticas sociales y estado de bienestar educación empleo ayudas sociales materias que tienen que ver directamente con la vida diaria y con la calidad de vida de los ciudadanos en definitiva con lo que usted denomina los intereses reales de los ciudadanos y aquí

se produce en sus planteamientos por un lado reniega del régimen jurídico económico de que nos dotamos y que nos permite como decía tener unos niveles

y por otro lado luego es usted el primero en apuntarse a solicitar

innovadores y derechos que no se dan en otras comunidades que no sé de donde puede buscar esas vías de financiación entonces yo quiero poner de manifiesto esa contradicción que muchas veces pues se puede presentar

en tercer lugar dice porque pretende también se opone porque pretende convertir la ley municipal en norma actualizadora de los derechos históricos en materia local derivados del régimen foral vasco

con el amparo y respeto de los derechos históricos vascos que están protegidos como decíamos por la disposición adicional primera de la constitución y con su actualización y ello va a permitir avanzar en el establecimiento en euskadi de un sistema de gobierno local propio y finalmente también dice que se opone porque respeta escrupulosamente la singular posición que asumen los territorios históricos

que se consolida a través de esta ley lógicamente de eso se trata pero como decíamos buscando el adecuado equilibrio entre los tres niveles institucionales de euskadi

upyd qué plantea nos lo ha dicho ya reiteradas ocasiones hoy también lo ha vuelto a explicar aquí plantean

y como dice en su enmienda de totalidad defendiendo todas las iniciativas que sean precisas para garantizar la mayor igualdad posible de modo que los impuestos que se paguen y los servicios que se presten sean semejantes en todo euskadi entendemos aunque no lo dice y por extensión uniformador en todo el estado español pero reiteradamente ha hecho estos planteamientos en esta cámara y como decía respecto al otro tema de la fusión de municipios se ha quedado

y el otro aspecto también plantea que es indispensable proceder a un ambicioso proceso de fusión y supresión de los municipios

lo planteó en el congreso y hoy mismo ha reconocido

soledad en esta materia tanto en esta cámara como en el congreso y a la vez

pues critica que no se contemple en el proyecto de ley municipal es decir que no tenga traslado sus planteamientos

absoluta soledad a un texto normativo que va a afectar a todos los ámbitos institucionales bukatzeko y tal y como os he venido manifestando en las distintas comparecencias en comisión

a hacer un esfuerzo para que esta sea la definitiva y euskadi pueda contar con la mejor ley municipal en el más breve plazo posible de tiempo besterik ez eskerrik asko

batalla parlamentario en relación a estas cuestiones y evidentemente esta enmienda de totalidad se rechazará por una mayoría de grupos que entiendo yo que pretenden dejar todo básicamente como está

nada importante cambie nosotros no estamos para esto nosotros estamos para cambiar profundamente

efectivamente como esto de reformar profundamente el entramado institucional suprimir las juntas generales de los territorios históricos suprimir las diputaciones forales o llevar a cabo un proceso de fusión de municipios ojalá fuéramos mayoría pero mientras estemos presentes en las diferentes instituciones vamos a seguir defendiendo estas ideas porque pensamos que son las ideas más justas y las ideas más necesarias para defender los intereses de los ciudadanos y sí

en esa enmienda de totalidad que nosotros hemos presentado están incluidos los argumentos de upyd que durante todo este tiempo hemos defendido y que ustedes evidentemente

pero están ahí recogidos perfectamente nuestros argumentos como no podía ser de otra manera yo no veo ninguna contradicción en los argumentos planteados por upyd pueden ser argumentos que usted no comparta es perfectamente respetable pero no veo yo que haya ningún tipo de contradicción al revés es pura coherencia con lo que hemos venido defendiendo durante todos estos años es pura coherencia

que pretende dejar todo básicamente como está y que es muy poco ambicioso y que es profundamente conservador eso hubiera sido lo contradictorio presentar esa enmienda de totalidad incluir en esa enmienda nuestros argumentos y defenderla es pura coherencia y es lo que seguiremos evidentemente haciendo usted dice que el propósito es en fin empezar cuanto antes los trabajos de la ponencia y efectivamente así será hoy mismo después se constituirá esta ponencia nosotros no tenemos como objetivo retrasar

no tenemos ningún ánimo boicoteador no tenemos ningún tipo de disposición a retrasar los proyectos de ley o a retrasar las ponencias que tengan que articularse en este parlamento todo lo contrario queremos que se trabaje más y mejor de hecho hay alguna serie de ponencias

su puesta en marcha por lo tanto no hay ningún ánimo boicoteador hombre lo que no admito es que usted venga a decir casi que upyd es el responsable de que no tengamos una ley municipal en el mes de julio no porque llevamos treinta y cinco años sin ley municipal

para que euskadi pueda tener una ley municipal porque han venido reclamando la necesidad y la urgencia de esta ley

tan importante que era nosotros llevamos en este parlamento seis años

un proyecto de ley municipal hasta este que se ha presentado ahora por lo tanto ninguna actitud boicoteadora lo que digo es que puesto que tan urgente y tan importante que tengamos una ley municipal lo que nosotros queremos es tener la mejor ley municipal posible y evidentemente no vamos a desaprovechar ningún tipo de debate para defender

en profundidad del entramado institucional efectivamente y este proyecto de ley y lo dice el gobierno lo que pretende es consolidar todo eso usted

se le ha olvidado leer la segunda parte de cada una de las frases que usted ha leído donde upyd viene a plantear qué es lo que debería hacer el gobierno

qué es lo que upyd defiende por lo tanto en fin retrasar los trabajos en absoluto que es otro de los argumentos planteado también por

votan a favor de esta enmienda de totalidad porque la ley municipal ya se ha retrasado suficiente tiempo claro

y quizás quiere decir que es una ley muy importante y puesto que es una ley muy importante queremos que se traiga el mejor proyecto de ley posible y esto evidentemente esto que se nos ha presentado no supone ningún cambio relevante por cierto algo que los diferentes grupos de la oposición han venido expresando

públicamente que efectivamente este proyecto de ley no supone ningún avance relevante usted pretende y ustedes pretenden cambiar este proyecto de ley vía

nosotros estaremos ahí debatiendo esas enmiendas parciales pero pensamos que no es suficiente presentar enmiendas parciales y que esas enmiendas parciales difícilmente cambiaran lo que nosotros queremos cambiar en relación a este proyecto municipal se nos ha dicho por parte de un grupo y de otro que nosotros pretendemos hacer desaparecer y suprimir ayuntamientos no sé si ustedes no entiendes bien o es que no miran un poco a su alrededor

de municipios es algo que todos los países de nuestro entorno lo han llevado a cabo en los últimos años no es suprimir nada es fusionar

mejores ayuntamientos para dar mejores servicios a los ciudadanos para prestar mejores prestaciones a los ciudadanos esto es lo que hemos venido defendiendo y lo que se ha hecho en todos los países de europa este es el proceso que defendemos tener ayuntamientos

para prestar mejores servicios y sí lo hemos venido defendiendo en el congreso de los diputados lo hemos defendido aquí lo hemos defendido cierto nosotros solos veremos si en los próximo tiempos esto cambia y

de este asunto que nosotros consideramos absolutamente relevante decía el portavoz del gobierno vasco que este es un proyecto de ley municipalista y foralista y efectivamente puede serlo nosotros preferimos

un proyecto de ley municipalista y no foralista que todo lo que queremos cambiar evidentemente no puede cambiarse con la aprobación de la ley municipal evidentemente

para llevar a cabo todos esos cambios que nosotros reclamamos desde la modificación de la constitución española hasta la supresión de las diputaciones forales

de las diputaciones provinciales o ese amplio proceso de fusión de municipios y tiene todo el sentido entiendo yo presentar todos estos argumentos también

a la ley municipal ya digo es un texto muy poco ambicioso que poco va a cambiar la realidad en euskadi no se trata de decir

finalmente se aprueba no se trata de cerrar el entramado institucional

de nada de eso sino se trata de tener las mejores leyes posibles y esta ley no supone ni un solo avance no supone ningún avance relevante

de ahí nuestra enmienda de totalidad ya digo lo repito lo decía antes nosotros seguiremos defendiendo que podamos tener la mejor ley municipal posible

las competencias a asumir por las corporaciones locales y esta no lo hace una ley municipal para garantizar la autosuficiencia financiera de las entidades locales

una ley municipal para reformar y modernizar la estructura de nuestra administración local y esta no lo hace y una ley municipal para situar a los municipios en el lugar que les corresponde y esta tampoco lo hace no hace nada de esto y desde luego no impulsa la fusión de municipios

plantee algún argumento en relación a su negativa para llevar a cabo ese proceso de fusión de municipios presente

algún argumento de peso para defender que no hay que fusionar municipios en euskadi o fuera de euskadi pero hágalo con argumentos presente algún dato relevante

no nos diga únicamente que este proceso solo lo defiende upyd no se trata de eso se trata de que usted defienda algún argumento algún argumento que

algún argumento y a partir de ahí podemos discutirlo en fin estos son nuestros argumentos estas son nuestras razones

estaremos presentes en esa ponencia defenderemos nuestras enmiendas parciales trataremos de tener la mejor ley municipal posible trataremos de hacer todo lo que sea necesario pero nosotros en ningún caso podemos dar el ok a un proyecto de ley

una oportunidad y que deja todo básicamente como está nosotros no somos un partido conservador ustedes sí y comprendo que no pretendan cambiar nada
pero nosotros queremos cambiar a fondo muchísimas cosas gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko bigarren txandara pasatuz

si quiere en cualquier momento se puede hacer pero sí queremos decir un par de cosas nos achaca que

en europa y nosotros pensamos que usted no ve lo que tenemos aquí quizás pueda ser debido como le decía el señor erkoreka

de este país y en segundo lugar es evidente

constantemente que partimos de concepciones distintas el pnv el partido nacionalista vasco va a cumplir ciento veinte años de historia en los cuales su objetivo ha sido siempre el mismo

conseguir las mayores cotas de autogobierno y mejorar la calidad de vida de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas que viven en este país mientras upyd

el mismo objetivo hay que reconocérselo en su ánimo uniformador pretende laminar de un plumazo todos esos derechos

y lógicamente pues nosotros nos oponemos radicalmente a ello y creo que la ciudadanía le está demostrando que tampoco

esta ley ha sido la asignatura pendiente de todos los gobiernos los sucesivos gobiernos de esta comunidad autónoma del país vasco han hecho dejación

una ley municipal desde luego aquí sí que no hemos sido nada pioneros eta lege honek

bertebrazioa osatzen du por eso décimos que esta ley no es una ley cualquiera esta ley es una ley fundamental para culminar la vertebración

y a nuestro juicio se ha perdido una oportunidad una clara oportunidad porque no se delimitan por una parte claramente las competencias de los distintos niveles institucionales

no se garantiza por otra parte el principio de autonomía local clarificando las competencias y su correspondiente financiación y la valoración del coste efectivo que es un concepto que nosotros hemos querido introducir en nuestras enmiendas no se incide suficientemente

no se ha preservado la singularidad foral de nuestras diputaciones porque podemos decir que el espíritu que impregna todo este proyecto de ley es un cierto menoscabo de estas peculiaridades plasmada en diversos aspectos que no compartimos

y en concreto del territorio histórico de álava y parece ser que este proyecto de ley

a aquellos que no quieren del todo salvaguardar nuestra identidad foral y la pregunta señor lehendakari señor erkoreka señores del gobierno

de este proyecto de ley en la discusión de las enmiendas

forales menoscabando nuestras singularidades forales de lo que tengo que decir que obviamente dependerá nuestra posición foral pero es que a la vez que se ha menoscabado diluido o rebajado las competencias forales no delimitado claramente las competencias de nuestros municipios aquí no se trata de ser municipalista o foralista porque creemos que el municipalismo vasco

el marco jurídico vigente la legalidad vigente y que está reconocida por lo tanto en la constitución en su disposición adicional

se trata de tener un municipalismo propio dentro de esa singularidad que es a lo que no ha atendido a alumbrar a visualizar este proyecto de ley hablaban de consenso efectivamente habrá que buscar el consenso porque las posiciones también son diferentes ese consenso que

ese consenso que en el consejo municipal tampoco fue posible porque fueron claras las discrepancias entre eudel las diputaciones y el gobierno y por eso también

tardó tanto en remitir un proyecto de ley a este parlamento también fueron muchas las alegaciones que se presentaron al anteproyecto de ley

no se han resuelto cuestiones que se tenían que haber resuelto y que en ese sentido como decía hemos perdido una oportunidad pero a pesar de ser críticos con este proyecto de ley y eso se plasma en las numerosas enmiendas que hemos presentado enmiendas parciales no enmienda a la totalidad pero sí ciento ochenta y dos enmiendas parciales queremos tener una actitud absolutamente constructiva porque si hay algún grupo que en esta cámara ha reclamado esta ley esta ley municipal absolutamente necesaria para cerrar el círculo de la configuración de nuestro institucional y competencial ese ha sido el partido popular

creemos que ya es hora de tener una ley municipal pero no una ley municipal cualquiera por eso en nuestras enmiendas plasmamos

con delimitar de forma más clara las competencias y su financiación porque no se delimitan de forma clara

al autonomismo de nuestros municipios dentro de esa singularidad

no lo han establecido así en este proyecto de ley

y en ese sentido también creemos que se ha perdido una oportunidad

vasco de políticas públicas locales no municipales eliminar órganos que son entes instrumentales y acarrean duplicidades claras como es la comisión de gobiernos locales y como no salvaguardar las competencia forales pero para garantizar

que tratar esta ley municipal en definitiva señorías votamos en contra de la enmienda de totalidad porque creemos que no es el camino el camino es intentar corregir los numerosos déficits deficiencias de este proyecto de ley y

en las sucesivas enmiendas presentadas por el grupo popular y veremos cuál es la actitud de este gobierno en la búsqueda de esos consensos consensos amplios

de estas características y consensos que de alguna forma no se han buscado hasta ahora y veremos también cuál es la posición del gobierno si va a ser de bajar las competencias

gracias presidenta los socialistas vascos queremos

que defina el marco de actuación de los ayuntamientos con criterios de modernidad de eficacia y sobre todo de servicio público porque no podemos olvidar que el municipio se repite muchas veces pero es muy cierto es la administración más cerca al ciudadano la primera puerta

euskadi siga sin tener este marco aunque todos sabemos perfectamente por qué ha sido una ley que ponga a los ayuntamientos en pie de igualdad de verdad con el resto de instituciones para prestar de forma eficaz a los ciudadanos los servicios de su competencia

y esta ley no puede esperar más y porque llevamos mucho retraso demasiado no podemos dilatar más su aprobación por el hecho

de un grupo que además no cuenta con representantes municipales quiera ralentizar la tramitación parlamentaria del proyecto con su enmienda a la totalidad todo para poder hacer su discurso

presentado por el gobierno vasco con distintas intensidades de crítica pero hemos renunciado a enmendarlo a la totalidad atendiendo a la necesidad de contar ya con una ley municipal y upyd no ha querido renunciar a hacer ese discurso el discurso

y en eso estamos este trece de julio del dos mil quince los socialistas podemos mejor que nadie reivindicar nuestra coherencia respecto a esta asignatura pendiente de la arquitectura institucional interna del país vasco en cuanto lo que hace referencia a los municipios

estando en el gobierno vasco y estando en la oposición podemos ratificarnos punto por punto en todo lo que dijimos en el pleno del treinta y uno de enero del dos mil trece cuando se debatió la toma en consideración de la proposición de ley municipal que presentamos los socialistas por lo tanto no es la primera vez que se debate esta ley en este pleno señor maneiro una ley que pedía que los ayuntamientos vascos tuvieran una ley propia que acabara con la indefinición actual y les dotara de competencias y recursos suficientes para atender a las demandas

reclamada por los propios municipios de todos los colores

con servicios como el abastecimiento de agua o las basuras o la asistencia social o el urbanismo

y tantas cosas más que atienden cada día los ayuntamientos vascos y en algunas ocasiones más de las deseables asumiendo competencias que no le son propias

suficiente para acometerlas nosotros creemos que los ayuntamientos

y creemos en la autonomía municipal que es algo más que un simple enunciado para quedar bien por eso discrepamos en muchas de las cosas que plantea el gobierno del pnv en el proyecto de ley y así lo hemos recogido en nuestras enmiendas

de esta ley eso que tanto le ha costado entender al partido nacionalista vasco más de tres décadas y que ahora asume como algo perentorio y nos alegramos del cambio de criterio

con las que pretendemos corregir las disfunciones que vemos del gobierno para cubrir lagunas que la ley tiene y borrar los resabios foralistas que desprende en favor de la eficiencia en la prestación de servicios públicos y un pequeño consejo señor erkoreka no se preocupe usted tanto por el tema foral o territorial aquí vamos a hablar de los ayuntamientos ya tendremos ocasión a la vuelta del verano porque reitero el compromiso de este grupo de presentar la ley el proyecto de ley de territorios históricos a la vuelta del verano y ese será el momento de que podamos abordar la reforma de verdad de la arquitectura institucional del país

de cooficialidad del euskera y el castellano de transparencia de participación y de todo eso vamos a debatir con puntos de encuentro amplios que vamos a buscar

socialista y por eso haremos esto más allá de iniciativas pensadas para ser

lo llamativo es que una vez conseguido mover a quien como el pnv no se ha querido mover en más de treinta años una vez logrado que los indecisos asumieran que esta asignatura es más que un reclamo político caso de bildu que se abstuvo en la toma de consideración en el dos mil trece de nuestro proyecto de ley municipal

dilatar la tramitación de esta ley que hasta hace cuatro días consideraba tan urgente como nosotros

entendemos que son meras excusas y por supuesto le reconozco el derecho

a la totalidad pero creo que debía de reflexionar si este intento de bloquear el debate se corresponde

nosotros hemos tomado la decisión de no bloquear esta ley de hacer realidad una ley municipal

no vamos a hacer lo que nosotros sufrimos la pasada legislatura los ciudadanos administrados por los nuevos ayuntamientos no se merecen esa actitud ni la que ha tenido el pnv hasta antes de ayer ni la que pretende abanderar upyd
a día de hoy muchas gracias eskerrik asko pastor jauna gai zerrenda